sailburu eta legebiltzarkideok egun on el pasado mes de enero este parlamento mostró su rechazo al anteproyecto de la ley de mejora de la calidad educativa y solicitó al gobierno español su retirada además instaba al gobierno vasco a defender el autogobierno la calidad de nuestro sistema educativo y los derechos lingüísticos y educativos contando con la comunidad escolar ordutik hona

hasteko asmoz tal y como hemos expresado en numerosas ocasiones el partido nacionalista vasco está

porque responde a un intento de centralización y uniformización de los sistemas educativos y no respeta la competencia exclusiva que euskadi tiene en materia educativa porque no tiene suficientemente en cuenta la realidad plurilingüe del estado y las realidades

porque tiene el objetivo de solucionar problemas que el sistema educativo vasco no tiene y trata de maquillar los malos datos del estado en aspectos como el fracaso escolar

del suficiente consenso social y político que entendemos son fundamentales para abordar una reforma como esta no sé qué harán el resto de grupos parlamentarios pero

va a trabajar duro para defender el autogobierno y el sistema educativo vasco y para ello nuestro grupo parlamentario presentará todas las enmiendas

qué actitud adoptará el gobierno vasco si la ley resultante de la tramitación parlamentaria vulnera las competencias que le corresponden a euskadi en materia educativa
y si es perjudicial para el sistema educativo vasco eskerrik asko eskerrik asko

datu gehiago titulados en secundaria en el estado un sesenta y cinco por ciento en euskadi un ochenta y dos coma nueve por ciento

en fp estamos doce puntos por encima eta azken adibide bat kezkatuta gaude euskadin gazteen ehuneko hamabosta

si la ley que salga del congreso es perjudicial para nuestro sistema educativo

el gobierno vasco utilizará todas las herramientas necesarias

por un lado para agradecer la respuesta y la determinación de la señora consejera y en segundo lugar para mostrar nuestra satisfacción y resaltar la oportunidad
de que a partir de la semana que viene vaya a reunirse con representantes de todo el sistema educativo vasco eskerrik asko eskerrik asko

pero le pediría que también fuera más clara en lo que es la justificación o la exposición de motivos de su pregunta a la que también me atengo porque lo que usted en realidad planteó fue que el gobierno incumpliera el objetivo de déficit no que aplicara el objetivo de déficit sino que incumpliera el objetivo del

yo le voy a reiterar que el gobierno no va a superar el límite de déficit hasta que se apruebe y le voy a recordar que el gobierno hace exactamente lo mismo

lo mismo porque por ejemplo la diputación foral de gipuzkoa ha asumido

que recoja aportaciones y propuestas lo estoy haciendo desde el primer día de mí mandato

el gobierno está trabajando para que en el mismo momento en que esta opción sea real podamos poner en marcha los proyectos compartidos de reactivación económica y generación de empleo

y me dice usted para las personas y me pone como contraposición para las personas el metro y a quién va destinado el metro o la línea tres del metro si no es a las personas

y a compartir los proyectos a desarrollar a valorar y valorados por nosotros en ciento ochenta millónes de euros

dos años hablando de que va acambiar el sistema y el modelo y en treinta años este país

a mi modo de ver dos modelos ha conocido dos modelos ya conoce dos modelos el que hace y el que deshace el que construye y el que destruye y nosotros el gobierno vasco vamos a seguir el modelo de construir este país me habla usted de debates y de foros

pero en paralelo vamos a seguir construyendo este país vamos a seguir abriendo la persiana cada día eso se hace concertando proyectos facilitando inversiones

reflexión sí pero acompañada de acción no vaya a ser que tengamos que esperar más de dos años y sigamos sin conocer un plan anticrisis como ocurre en el territorio de gipuzkoa

eskatu egiten diguzue una idea para terminar el gobierno va a tener la oportunidad de destinar doscientos cuarenta y cinco millónes a estimular la economía

hemos remitido proyectos para escuchar y compartir juntos avanzaremos más y le puedo garantizar que las inversiones se van a poner en marcha el país necesita estímulo y lo tendrá eskerrik asko

de mayo asistimos a un importante despliegue de la ertzaintza en ondarroa para detener por orden judicial

quiero aprovechar la ocasión para enviar un mensaje de apoyo y felicitar a la ertzaintza por la actuación de ese día

que protagonizaron quienes trataban de impedir que la ertzaintza como policía integral

cómo la portavoz del grupo eh bildu de esta cámara actuaba de intermediaria

digo intermediaria porque anunció diversas conversaciones de ese mismo día con la consejera de seguridad de su gobierno en las que según la portavoz de eh bildu

que evitara brotes de violencia en el transcurso de la operación y he dicho supervisora de la operación porque todos pudimos escuchar cómo dicha portavoz

el desalojo amenazando incluso con llamar a la consejera si no deponía su actitud desde el punto de vista informativo la actitud de la portavoz de eh bildu dio para mucho más

la conclusión es que ante la ciudadanía vasca la portavoz de eh bildu apareció como garante a petición del gobierno vasco de que en el desarrollo del operativo no iban a producirse actos de violencia y lo que es más grave aún la percepción de que esa interlocución había inferido capacidad de mando sobre los agentes que estaban actuando

con la que nos quedamos todos los que por un medio u otro hicimos seguimiento de la noticia a día de hoy no tenemos una explicación por parte del gobierno vasco que desmienta esta percepción de los hechos

para intervenir en una actuación policial estamos ante una grave decisión política que no puede tener otro responsable que no sea usted señor lehendakari por eso le pregunto

negociar con la portavoz de eh bildu las condiciones en que se debe producir la actuación policial
para atender un mandato judicial de detención eskerrik asko unzalu jauna

dado que usted cita una conversación en su pregunta entre la consejera y una portavoz de un grupo parlamentario

sea la consejera quien pueda dar explicaciones porque está ligada también a una quinta pregunta en el orden del día sobre esta misma cuestión en todo caso señor

yo como lehendakari respaldo absolutamente la actuación de la consejera de seguridad

y además felicité al departamento de seguridad y también a la ertzaintza

agradezco sus explicaciones lo cierto es que tampoco nos ha

de que fue la propia consejera de seguridad la que fue la interlocutora directa pero en cualquier caso admitiendo sus explicaciones y espero la respuesta que luego nos dé la señora consejera yo le haría dos precisiones con respecto a este asunto la primera que en relación con la relevancia mediática

hubiera sido necesario una respuesta inmediata y contundente por parte del gobierno y la segunda porque lo que aquí venimos no es a lo que la consejera le dijo a la señora portavoz de eh bildu

y los medios de comunicación reiteraron que efectivamente

trascripción de la conversación que tuvo la señora mintegi con un mando de la ertzaintza dice estefanía beltrán de heredia me ha llamado por teléfono y me ha dicho que en cualquier momento la llame

un desalojo de esa manera y si lo vuelvo a ver llamo a estefanía beltrán de heredia señor lehendakari lo que estamos aquí

tratando de plantear es si realmente hubo encargo por parte de su gobierno a la señora

intermediaria y supervisora de la operación policial o no en cualquier caso si lo hubo para nosotros sería

grave precedente y bueno pues espero las explicaciones de la señora consejera muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko

usted está planteando negociar condiciones ha hablado de una conversación

la señora mintegi como posible

operación pues tengo que decirle que la consejera de seguridad es la que está aquí presente y las negociaciones a las que usted hace referencia no fue nada más que una conversación telefónica conversación telefónica que se produjo en la mañana del día quince

el centro de coordinación del operativo policial me había informado de la presencia de parlamentarios y parlamentarias de eh bildu en los aledaños de la concentración de ondarroa y me informaron que la propia señora mintegi

se había dirigido a uno de los mandos a uno de los responsables del operativo

ocurriendo consideré oportuno llamarle llamarle en primer lugar para interesarme por el papel que estaban ejerciendo allí miembros de este parlamento en los aledaños de aquella concentración que pretendía evitar o al menos dificultar la detención

que efectivamente habíamos ido a detener a la señora alkorta que habíamos ido a practicar una detención ordenada y adecuándonos

y por último le advertí de algo que ya se había comunicado a través de la megafonía por parte de la ertzaintza que existía de que hubiera tanta gente acumulada en un puente de una estructura antigua y le pedí responsabilidad responsabilidad apelando a su condición de parlamentaria una conversación que en nada

y en este sentido señor unzalu no tengo nada que reprocharme hablé ese día y hablaría mil veces igual que hablé con la señora mintegi portavoz del grupo parlamentario eh bildu

señor unzalu es especular con llamadas telefónicas

creo que ocasión tendrá de contarnos conversaciones telefónicas

acuerdos pactos visitas negociaciones y frustraciones que tenga su formación política en toda su trayectoria de relación con la izquierda abertzale y hasta seguramente en algunos casos podríamos estar de acuerdo

haya satisfecho la curiosidad que tiene en torno a aquella conversación eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako laugarren puntua galdera

gracias señora presidenta lehendakari en una realidad que apunta a una entrada más tardía que en otros lugares pero igual de dura las consecuencias de la crisis
económica se están percibiendo en los datos de desempleo o caída de la recaudación de las administraciones de manera notable

que ha impedido tomar medidas a tiempo de hecho las previsiones de ingresos fiscales para el año dos mil trece tampoco se están cumpliendo

qué medidas piensa tomar para adecuar la realidad del gasto a la realidad del ingreso muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko

ocasión de compartir también con usted el diagnóstico de la situación económica de euskadi y las propuestas base las propuestas base del gobierno para afrontarla en ningún momento señora quiroga en ningún momento he negado la crisis

he realizado desde entonces planteamientos para afrontar la situación tanto en euskadi como en el estado pero no es el caso reiterarme en ellos el nuevo gobierno el gobierno vasco

me remito a los datos del primer trimestre estamos cumpliendo el límite de déficit y mantenemos nuestro compromiso con la consolidación fiscal por demás

no vamos a gastar más de lo que tenemos y además del esfuerzo por mantener el empleo público y los servicios esenciales de las llamadas políticas sociales sí vamos a invertir en medidas de estímulo para reactivar la economía y crear empleo la economía productiva del país lo necesita conoce usted señora quiroga el

lo cierto es que ahora nos golpea con fuerza fundamentalmente por las dificultades que encuentran nuestras empresas para

encontrar esos mercados de exportación pero sin duda es el paro el principal

y es la rigidez normativa y la estructura económica es el paro el epicentro de nuestros problemas

en el capítulo de gastos el hecho de que haya más parados porque aumenta las necesidades de gasto y atención si no hay empleo no hay irpf si no hay consumo no hay

no hay impuesto de sociedades y qué podemos hacer en estas circunstancias señor lehendakari qué tenemos que hacer para superar este trance

no podemos invertir por encima de nuestras posibilidades debemos gastar mejor el gasto hay que racionalizarlo y debemos sobre todo crear empleo señor lehendakari ustedes llevan doscientos días

y no ofrece que demuestra ciertos miedos miedos que tienen que ver con no querer asumir riesgo alguno el riesgo está ahí por supuesto

difícil el riesgo que asumen los líderes a quienes se valora en función del acierto en los riesgos que corren pero lehendakari el mayor riesgo

pero sí para los vascos el riesgo de no arriesgar es el riesgo para los ciudadanos es el riesgo para nuestro tejido empresarial que exige actuaciones y guías es el riesgo que asumen todos los días los ciudadanos tratando de mantener las persianas abiertas

es el riesgo que asumen los empresarios es el riesgo que asumen los emprendedores es el mismo riesgo señor lehendakari que yo le pido que asuma para liderar este país con un trabajo serio con rigor y con capacidad de análisis pero sobre todo

eso es lo que le estamos pidiendo desde el partido popular porque es

señor lehendakari nosotros estamos dispuestos a asistir a todas aquellas convocatorias en las que el lehendakari

pero necesitamos pasar de los análisis a las propuestas a los papeles a los números

con propuestas también del partido popular que ayuden y recuerde señor lehendakari que el liderazgo tiene que ver con la influencia que usted genera en los demás

no se preocupe la próxima ocasión vendré habiendo recontado

habré recontado ya las veces en las que usted ha hablado de falta de liderazgo de no asumir el desgaste de la inacción de la necesidad de acción etcétera

para demostrarle que es el discurso en el que están anclados hombre me ha llamado la atención en su planteamiento la referencia

más de un año con el decreto de reforma laboral y habla usted de la rigidez normativa

y le he contestado y me vuelve a plantear recuperar la sensatez

está adecuando sus gastos a la realidad de sus ingresos el gobierno anterior con su apoyo

no lo hizo no lo hizo por más que ayer en esta misma tribuna un parlamentario de su grupo se jactara

en la correcta gestión de haber multiplicado la deuda por diez en la pasada legislatura el gobierno anterior señora quiroga con su apoyo gastó más de lo que tenía lo hizo gracias al aval de su partido que aprobó todos sus presupuestos también el del año pasado

ahora bien señora quiroga nos corresponde mirar adelante tiene usted una propuesta para proceder a una reforma fiscal tiene usted una propuesta para un plan conjunto de lucha contra el fraude son propuestas a la espera de su respuesta señora quiroga tiene usted el plan de empleo propuesto por el gobierno conoce el avance en los proyectos compartidos con las diputaciones son doscientos cuarenta y cinco millónes de estímulos señora quiroga

señora consejera efectivamente como se ha dicho antes el pasado día quince de mayo miércoles se procedió por parte de la ertzaintza a la detención

alkorta condenada a cinco años de cárcel por colaborar con eta tres parlamentarios de eh bildu participaron

impedir la detención de una delincuente pretendían nada más y nada menos que tratar de impedir la detención de una

esto lógicamente deja muy claro

por parte de varios partidos políticos un acto pacífico en absoluto puede ser considerado un acto pacífico intentar impedir la detención de un

que ayer en llodio hubiera habido una concentración que hubiera tratado de impedir la detención

imagínese que hubiera ocurrido esto pues bien

intentó en ondarroa que se impidiera la detención de una delincuente por lo tanto estamos ante cualquier cosa menos un acto pacífico nos parece ciertamente curioso que los parlamentarios de eh bildu aparecieran en el día y a la hora

lo cual demuestra que tenían conocimiento de ello y además vuelve a demostrarse la conexión de eh bildu con eta y nos parece esperpéntico que la portavoz de eh bildu en este parlamento la señora laura mintegi dijera a los ertzainas allí presentes que había hablado con usted y que tenía su número de teléfono

le llamaría nos parece un absoluto escándalo nos parece

estas cosas a veces da la sensación de que solo ocurren en euskadi es

con usted a primera hora de esa misma mañana le informó usted de la hora de la operación policial para detener a la delincuente negoció con ella le explicó usted previamente cómo se iba a desarrollar el operativo le exigió a usted algo la señora

privilegiada se comprometió usted a algo con ella y cómo va a actuar en próximas ocasiones va a estar otra vez allí

a usted o usted pidiéndosela a ella esto necesita una aclaración pública señora consejera gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

y le voy a repetir brevemente lo que ya he relatado anteriormente en la respuesta que he dado al señor unzalu mi conversación con la representante con la portavoz del grupo parlamentario eh bildu fue en la mañana del día quince de mayo justo

la presencia de los parlamentarios de eh bildu

ellos mi llamada a la portavoz como he dicho anteriormente de eh bildu fue para interesarme por su presencia por la presencia de parlamentarios y parlamentarias

para certificar que íbamos a detener a la señora

a hacer esa detención advertirle que actuaríamos como estaba ordenado y ajustándonos a las resistencias que pudiéramos encontrarnos y advertirle de los riesgos como he dicho anteriormente que podía representar tanta gente en aquel

esta fue la única comunicación que yo mantuve con la señora

de toda aquella mañana y anteriormente a ese operativo

previa por tanto a partir de ahí las valoraciones que usted considere y las elucubraciones que ustedes quieran

el operativo policial funcionó y funcionó correctamente y el objetivo era detener a la señora alkorta

y desde luego ni los parlamentarios de eh bildu ni ningún otro parlamentario tenía conocimiento de cuándo se iba a realizar la operación porque la operación

se atiende justamente a criterios policiales nada más no tenga otra duda señor maneiro eskerrik asko beltrán de heredia andrea

claro señora consejera fue casualidad que ese día por la mañana

los tres parlamentarios de eh bildu efectivamente no sabían absolutamente nada eso no se lo cree absolutamente nadie señora consejera mi valoración es que todo esto es un absoluto

este es el resumen que hace un servidor y que hace upyd esto no puede volver a repetirse a nosotros nos parece

de parlamentarios de eh bildu en ondarroa tratando de impedir la detención de una colaboradora de eta exige la aplicación estricta de la ley de partidos

decisión política y para próximas ocasiones le pido y le exijo más diligencia más inteligencia más contundencia y menos

más diligencia más inteligencia y más defender el estado de derecho esto es lo que

no me va a exigir con quién hablo y con quién no hablo no es usted quién para imponer las conversaciones a nadie y menos conversaciones privadas señor maneiro

si este departamento mantuvo comunicación para informar del momento de la detención

le he dado los detalles de la conversación y eso son los detalles reales de la conversación desde luego la fe

eso está claro ya le he comentado los detalles pero en cualquier caso no es usted quien va a coartar

relacionarme de expresarme y de hablar con quien tenga que hablar le he comentado los detalles de esa conversación y desde luego ya le he dicho que los despliegues policiales el momento de la operación el cómo se realiza responde a tácticas puramente policiales ni siquiera esta consejera decide en qué momento se va a practicar la detención ni si quiera es una decisión

no es una decisión política es una decisión estrictamente policial y en este sentido también quiero agradecer y aprovecho para agradecer el comportamiento

la eficacia y la eficiencia del operativo

unen las fiestas no dividen las fiestas se celebran son expresión de la personalidad de un pueblo

en este caso estamos ante una fiesta que divide se produjo división hace tres años cuando se aprobó la ley

y a mi modo de ver se produciría división también en el caso de promover su derogación

de carácter artificial que intentó trasladar al parlamento un consenso mayoritario

pues no era fruto de un consenso social lo cual usted ha expresado también correctamente el parlamento en aquel momento no era fiel reflejo de la sociedad y eso permitió aprobar una ley que hoy solamente tres años después a mi modo de ver no hubiera tenido el más mínimo recorrido parlamentario y ahora

nos vuelve a traer el debate a esta cámara mire desde el máximo respeto que tengo a este parlamento

una pregunta fruto de una sensación seguramente estrictamente personal

a los que venimos asistiendo en esta cámara tienen poco que ver con las preocupaciones de la ciudadanía este debate

genera nuevamente división traslada a la sociedad un mensaje de conflicto da la impresión de que no le resolvemos los problemas sino que se los creamos tal y como dice la pregunta quiere saber la intención del gobierno vasco con respecto a la eliminación

pero desde luego no ha sido nunca un día de celebración compartido por la mayoría de la sociedad vasca no lo ha sido seguramente porque a pesar del indiscutible valor

la sociedad vasca el desarrollo estatutario del bienestar de su ciudadanía de su autogobierno una parte de la sociedad aquella que no duda cuando trata de sacar provecho de él y beneficiarse de los bienes que ha traído el estatuto

como siempre ha hecho no sé usted señor urizar donde se coloca en esa situación y porque otra parte de esta sociedad que invoca el estatuto

no ha dejado nunca de tratar de frenar su desarrollo o limitar las competencias que ya habíamos adquirido como usted bien ha expresado otros en cambio desde hace décadas apostamos primero por

después por su aplicación y por su desarrollo pleno aún estamos lejos de lograrlo y como decía el representante del partido nacionalista vasco en el debate de la ley dos barra dos mil diez

es un sarcasmo que quienes niegan el desarrollo del estatuto hayan elegido el día de su aprobación como festivo la decisión se articuló nada menos que mediante una ley

fue un acuerdo legal cierto aplicando las mayorías parlamentarias necesarias pero en un órgano legislativo como decía antes en el que no estaba representada toda la sociedad vasca por lo tanto visualizó la división

debe estar normalmente vinculada a un sentimiento o a una emoción mayoritaria

para compartir no para separar ni diferenciar la elección del veinticinco de octubre como fiesta del país vasco vino a ahondar en la diferencia en lo que nos separa no en lo que nos une porque por mucho que en el preámbulo de la ley diga que el estatuto de gernika siga constituyendo a día de hoy

al menos en el último siglo y medio y por mucho que diga por primera vez en la historia algo evidentemente discutible alaveses guipuzcoanos y vizcaínos compartimos una organización institucional que ha hecho posible el desarrollo de la autonomía vasca por mucho que insista en todo esto

aún no han cejado en su intento de no desarrollarla de recortarla de discutir el marco competencial que representa mire se lo voy a decir de forma clara nosotros no somos partidarios de la celebración del veinticinco de octubre

porque nos recuerda una fecha también muy importante para este país la abolición de los fueros del año mil ochocientos treinta y nueve y porque nos recuerda

que tanto se invocan en algunas ocasiones sigue claramente inconcluso no estamos de acuerdo con la fecha del veinticinco de octubre como día del país vasco pero no creemos que sea el momento de reabrir

ejercicio del dos mil catorce de cara al año dos mil catorce un nuevo debate

que creemos que no conecta en estos momentos directamente con las necesidades que tiene la sociedad porque hacer un debate público para derogar esa ley creemos que llevaría solamente a evidenciar nuevamente la diferencia y el desacuerdo

entiendo por tanto dada la transcendencia que ustedes han decidido dar a este asunto

para eh bildu definir una fiesta en el calendario es un asunto vital algo que en treinta años no ha tenido ninguna importancia como lo fue también vital en la legislatura anterior para otros partidos que optaron por seguir y desarrollar la misma línea que ustedes parecen querer seguir ahora mire durante el mes de junio va a presentar su calendario legislativo tal y como está comprometido por parte del lehendakari ante este parlamento

un proyecto de ley que modifique la ley dos barra dos mil diez y todo esto reconociendo que este gobierno insisto considera un error tratar de definir mediantes leyes los sentimiento de identidad de las personas

euskadi somos una sociedad plural con sentimientos de pertenencia plurales creemos que una mayoría parlamentaria

sentimientos no consideramos acertada esta ley la consideramos profundamente equivocada así lo expuso el partido nacionalista vasco durante su tramitación en el parlamento y hoy en nombre del gobierno vasco lo reitero en esta cámara

también le digo ya que usted lo menciona en su pregunta que para los que

ha sido un instrumento de desarrollo de bienestar

para los que creemos que es necesario su actualización para los que creemos que es necesario un nuevo estatus político estoy convencido

que declarando un día festivo en su nombre con cumplirlo o intentar que el estado lo cumpla sería más que suficiente eskerrik asko

eztabaida eta banaketa yo estoy de acuerdo con usted absolutamente de acuerdo en que la fecha elegida fue una fecha impuesta por una mayoría

evidentemente pero he insistido en mi primera intervención que es una fecha que no conecta con la realidad social de este país no tengo ninguna duda

en ese sentido este gobierno no rehuye el debate de buscar una fecha adecuada

en que las fechas están para unir en que las fechas son motivo de celebración debiéramos ser capaces de trasladar a esta sociedad algo más

la mera derogación de una ley que es lo que usted está pidiendo porque en su interpelación se pide que el gobierno actúe

es esta cámara porque no podemos olvidar que no podemos derogar mediante decreto lo que este gobierno ha aprobado mediante ley y el gobierno en las próximas semanas

porque tiene obligación de hacerlo porque antes del treinta de septiembre tenemos que tener determinadas cuáles son las fiestas laborales para que los municipios puedan determinar

la normativa les otorga a los mismos y para que se puedan realizar los calendarios laborales en todo el ámbito laboral del país va a hacer eso

será fiesta nuevamente porque no tenemos tiempo material en estos momentos para modificar esa ley pero por algo más importante porque creemos que no es suficiente con derogar la ley porque lo que este parlamento debe hacer y por lo que este gobierno debe abogar es por la búsqueda de un consenso mayoritario y de un consenso mayor que el que tuvo esa ley dos barra dos mil diez del veintidós de abril y porque en eso

empeñar en ese sentido hemos trasladado que no nos gusta la fecha que no compartimos la fecha y hemos dado razones quisiera yo

cuál cree que es la fecha que merece ser celebrada

por esta comunidad insisto en que el gobierno está por la labor de buscar esa fecha de coger ese guante

trasladar a la sociedad que somos capaces de llegar a acuerdos y que hemos dejado atrás la fórmula de buscar la división y de trasladar a la sociedad meramente el conflicto

sí gracias presidenta señor lehendakari los ingresos de las diputaciones forales

señor lehendakari la situación no mejora empeora se está incrementando el paro disminuye la recaudación empeora la situación económica estamos cada día peor los ciudadanos vascos están cada día peor y están cada día más preocupados por la situación económica que estamos sufriendo

ejercicio los ingresos reales han descendido un tres coma ocho por ciento en el país vasco lo que supone que el conjunto de la administración pública haya perdido ciento veinte millónes de euros en ingresos en comparación con el mismo período

la caída es más importante si se compara con el objetivo fijado en los presupuestos públicos para este año elaborados

y un aumento de los ingresos del tres coma siete por ciento así en el primer cuatrimestre la desviación entre la realidad y las previsiones presupuestarias se aleja ya

y pese a la posible relajación del déficit obliga a su gobierno le obliga a usted a tomar decisiones de manera urgente y sin más demora en lugar de impulsar nuevos recortes sociales tal situación debería llevar al gobierno a impulsar reformas de calado

que salvaguarden el estado del bienestar y los intereses de los ciudadanos y que nos permitan salir cuanto antes de la crisis económica y poder crear empleo este es

para no tener que impulsar recortes sociales sin embargo usted mareando la perdiz sigue inactivo sigue posponiendo todas las medidas que euskadi necesita al menos las más importantes se siguen posponiendo medidas indispensables y pospuestas durante años y que a día de hoy son mucho más urgentes

los ingresos de las diputaciones se situarían ochocientos ochenta y seis millónes de euros por debajo de lo presupuestado en este caso el gobierno vasco tendría seiscientos veinte

había estimado afortunadamente la relajación en el techo de déficit puede permitir es cierto recurrir a un endeudamiento adicional para lograr conseguir

millónes de recursos adicionales en ese escenario el gobierno vasco estaría obligado a acometer recortes por un importe cercano a los doscientos noventa millónes de euros nosotros le pedimos reformas decisiones políticas para no tener que impulsar recortes sociales contra los ciudadanos lo cierto es que la situación puede ser exactamente la contraria de la que predecían eh bildu y el partido socialista

seguramente habrá menos y ya digo hay que impulsar reformas para no tener que impulsar recortes y hablamos de efectivamente reforma fiscal hablamos de lucha contra el fraude hablamos de poner en marcha ya

hablamos de la revisión profunda del entramado institucional pero hacerlo ya hacerlo ya y luego podemos hablar de esta ponencia con más tiempo quizás

que no es tiempo de ponencias la ponencia ya funcionó durante la pasada legislatura la ponencia ya hizo todo lo que tenía que hacer la ponencia ya dio de sí

reformas para revisar el disparatado entramado institucional que tenemos para salir mejor de la crisis para tener más recursos para ceñirnos y centrarnos en lo que realmente importa a los ciudadanos

empresarial se nosanuncia otra vez un plan de redimensionamiento del sector público empresarial que este parlamento al gobierno vasco que presentara antes del treinta de junio usted lo anuncia para julio en todo caso hay que aplicarlo ya urge es urgente y desde luego

innecesario es curioso y lo digo con toda humildad pero son indispensables todas aquellas medidas que upyd viene planteando desde el año dos mil nueve algunas de ellas

especialmente algunas de ellas en solitario y especialmente algunas de ellas en solitario a comienzos de la legislatura anterior y me refiero a todas estas medidas

el partido nacionalista vasco y algún otro grupo siempre votaban en contra ya digo reforma fiscal lucha contra el fraude plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal

reducción drástica de los chiringuitos reducción drástica de gasto innecesario todas estas son las medidas que euskadi necesita y precisamente

las que ustedes señalaron en la reunión mantenida durante esta semana pero sin concretarlas pero sí que es cierto que ustedes señalaron estos epígrafes y ya digo son indispensables todas estas medidas para poder salir mejor de la crisis para poder dedicar

poder destinar los recursos públicos a lo importante no a soportar administraciones inútiles o ineficientes

duplicidades o ineficiencias no a financiar sociedades públicas innecesarias sino a garantizar el estado del bienestar las inversiones productivas

y autónomos por eso son indispensables todas estas reformas pero no basta con señalarlas en un epígrafe hay que concretarlas y

para llevar a cabo todas estas reformas ya digo pospuestas durante años pero imprescindibles a día de hoy antes eran indispensables ahora son

las apuntó usted en la mesa de partidos pero hay que concretar medidas apoyos y llevarlas a cabo y el parlamento es el lugar adecuado para ello por eso nosotros hacemos esta interpelación más allá de lo que

en la mesa de partidos lo importante es que estas cuestiones se traigan a este parlamento en nuestra opinión usted y su gobierno están

y con ello agravando la crisis usted parece que no tiene prisa pero los ciudadanos sí y por esto le preguntamos por las medidas que su gobierno se plantea tomar ante la grave crisis económica en la que nos encontramos y el mal comportamiento de la recaudación durante el primer cuatrimestre del año cuándo va a impulsarlas

apoyos tiene para poder impulsar todas estas medidas gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

que su pregunta me sonaba le dije que me había preguntado lo mismo en febrero en marzo

la diferencia es que ahora me ha preguntado usted lo mismo dos veces en mayo

que yo personalmente y de alguna manera usted así lo ha reconocido le expuse este pasado martes como le dije hace quince días hoy también le voy a responder

toda mi consideración quiero agradecerle que tal y como entonces le solicite haya tenido usted a bien bajar el tono de su presentación así me lo ha aparecido en comparación con otras intervenciones anteriores

oinarrizko bost adostasun proposatuz hace quince días por lo tanto le expuse las medidas adoptadas por el gobierno ya supe entonces señor maneiro que no le parecerían suficientes porque estamos instalados en los mismo discursos desde el

hoy me vuelve a preguntar qué medidas voy a impulsar me pregunta lo mismo y le respondo lo mismo señor maneiro las bases y las propuestas están sobre la mesa usted las conoce de primera mano recogidas en el documento que le entregué este pasado martes

para la reforma fiscal para poner en marcha un plan integral de lucha contra el fraude

para la reactivación económica y la creación de empleo me habla usted también

y de la ponencia para el análisis del entramado institucional que yo le planteo este martes también ligada a lo que pueda ser el análisis del autogobierno y de

y es una ponencia en todo caso a la que usted se refiere que ya está aprobada en este parlamento desde hace cuatro meses no es competencia del gobierno vasco será correspondencia a los partidos políticos o a sus grupos parlamentarios empezando por usted mismo el trabajo en esa ponencia aprobada en esta cámara

de lo que pueda ser la derivada también del entramado institucional y su afección

si me habla usted de perder el tiempo y nos referimos a la ponencia aprobada hace cuatro meses

pues apliquémonos el cuento dice usted en todo caso señor maneiro en lo que es la presentación de su interpelación que soy optimista y lo liga con el optimismo supuestamente por la decisión de la flexibilización en el objetivo del cumplimiento del déficit no confunda diciendo que soy optimista ahora por la posible flexibilización del objetivo del déficit no

soy optimista señor maneiro ante la capacidad de salir bien de esta situación soy optimista señor maneiro soy realista porque veo la realidad

para autónomos y profesionales de seiscientos millónes de euros lo hemos aprobado veo que el gobierno ha aprobado un plan de empleo con sesenta y cuatro medidas

mil ochenta millónes de euros de inversión este año veo que el gobierno va a poder invertir doscientos cuarenta y cinco millónes más en cuanto se relaje el límite de déficit

veo que este mismo martes el gobierno ha aprobado una partida de cuarenta y dos millónes de euros para ayudar a las empresas vascas que buscan abrirse a nuevos mercados y como veo todo esto y a pesar de que ustedes sigan criticando la inacción porque veo todo esto soy realista y sé que este país va a conseguir salir de la recesión superar esta cuestión y volver a crear empleo hori dena maneiro jauna

sí gracias lehendakari y seguiremos insistiendo

preguntas de hecho no me imagino ninguna interpelación ni pregunta más importante en estos cinco meses de gobierno o cinco meses y medio que preguntarle a usted cuáles son las medidas que piensa tomar para salir de la crisis si usted

si quiere usted conjuntamente pero no me imagino ninguna pregunta ni ninguna interpelación más importante que esta que es preguntarle a usted qué medidas va a tomar y cuándo las va a tomar y qué apoyos tiene para poder tomarlas para sacar a euskadi de la situación económica en la que se encuentra

nosotros seguiremos insistiendo el martes es cierto que telegrafió los epígrafes

las medidas necesarias es cierto también es cierto que no se concretaron deberán concretarse y en todo caso señor lehendakari

donde deben explicarse por lo tanto no se hagan ustedes los remolones cuando les hacemos este tipo de preguntas están bien todas las mesas de partidos que sean necesarias pero lo importante en este parlamento aquí estamos los representantes de los ciudadanos usted decía estas medidas están sobre la mesa sí pero es que no se aplican no se terminan de aplicar ninguna de las medidas que ustedes mismos parece ser que en los últimos tiempos están considerando como las necesarias no se aplican este es el asunto que no se aplican

o porque no han conseguido la confianza del resto de grupos por lo tanto están encima de la mesa pero no terminan de llegar mientras tanto se lo recuerdo se incrementa el paro baja la recaudación la situación económica empeora con lo cual yo estoy en la obligación de volver a preguntarle por estas medidas alguna cosa ha hecho sí claro en cinco meses y medio de gobierno

las más importantes no y además insisto sigue incrementándose el paro baja la recaudación y la situación económica es cada vez peor

de la situación en la que se encuentra todas aquellas medidas a las que el partido nacionalista vasco se ha venido oponiendo durante años y que nosotros hemos venido defendiendo no tenemos ningún problema en que si ustedes plantean medidas que puedan ayudar a salir de la situación de crisis nosotros vamos a poder apoyarlas y a seguir siendo exigentes

con toda humildad y con nuestro único parlamentario con nuestro único escaño intentar obligarles a ustedes a aplicarla esta es nuestra forma

no pierdan ustedes más el tiempo han pasado ya cinco y medio lo importante es qué piensa hacer si tiene claro si se cree estas medidas que anuncia cómo las concreta y con quién

e insisto reforma fiscal le recuerdo que este parlamento ya se ha posicionado a favor de que sea aquí donde pueda acordarse la política fiscal lucha contra el fraude

ustedes hace unos años lo negaban absolutamente ahora parece que ponen encima de la mesa un plan integral veremos cuándo se concreta y cuándo se pone en marcha reforzamiento de los mecanismos de colaboración coordinación e intercambio de información

hasta dónde piensan ustedes llegar en esto a qué se comprometen plan para el redimensionamiento y racionalización del sector público empresarial urge urge antes lo negaban que fuera necesario claro por eso no nos fiamos

ahora dicen que van a plantearlo veremos cómo y cuándo y se lo exigimos que traiga aquí este plan cuanto antes y revisión del entramado institucional

por razones que nosotros consideramos políticas hay quien intenta posponer la puesta en marcha de esta ponencia para nosotros

no creemos que tenga ya demasiado sentido lo que hay que hacer es reformar la ley de territorios históricos y en ningún caso lo que se puede hacer es pretender mezclar esta ponencia para reducir duplicidades con otro tipo de asuntos que usted ha venido a plantear intentar mezclar este asunto
el autogobierno esto no puede ser porque esto no fue lo que aprobó el parlamento gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

que usted y ustedes quieran imputar al gobierno al gobierno vasco

y que se ha puesto en marcha cuando se ha puesto en marcha que quieran ustedes imputar a este gobierno vasco

el descenso de la recaudación etcétera pues está muy bien pero creo que compartirá conmigo que no se corresponde con lo que es la realidad de la responsabilidad

insisto usted ha dicho una cosa y la contraria habla de lo que es la ponencia de lo que son las medidas para la reforma institucional

yo le pediría que usted tenga en consideración que algunas de las reformas o todas ellas tocan lo que pueda ser la necesaria reforma del estatuto y por eso el planteamiento de que también hablemos del estatuto como herramienta de autogobierno hacia fuera

usted decía antes que afortunadamente todas las medidas que ha planteado upyd se están tomando en consideración hombre decir todas y decir por lo tanto que también

insisto en que hemos tenido ocasión de encontrarnos ya en varias ocasiones

que usted ha reiterado hoy aquí y si me permite en su radiografía de situación añadiría un dato que considero importante le voy a pedir que incluya también la evaluación del cumplimiento del déficit al que me he referido en una pregunta anterior

de un gobierno vasco que está cumpliendo que está siendo capaz de garantizar los servicios públicos esenciales para la ciudadanía en un momento de menos ingresos y creo que esto es gestión y segundo en el encuentro de este martes hemos debatido sobre unas bases mínimas unos consensos básicos y un procedimiento para avanzar yo no voy a juzgar ninguna posición específica ni previa ni posterior al encuentro

sinceramente que hemos dado un paso necesario el primero no lo habíamos hecho con anterioridad estamos haciendo lo que tenemos que hacer señor maneiro porque la situación económica

la sociedad nos demanda que seamos capaces de compartir un proyecto para euskadi y yo es lo que voy a seguir intentando y propiciando porque tenemos que sacar este país

pero lo vamos a hacer y euskadi va a salir adelante usted podrá seguir hablando de falta de concreción señor maneiro

el plan de empleo las medidas de estímulo las ayudas a la exportación propuestas concretas de acción usted tiene unas propuestas muy detalladas también hablan

de los nuevos tramos de la tarifa general o de las retenciones en el caso del irpf hablan de las deducciones de los incentivos o de los regímenes especiales en el impuesto de las sociedades hablan del impuesto de sucesiones o donaciones de los tipos

en energía depósitos o juego hablan de endurecer el régimen sancionador o ampliar las obligaciones de suministro de información en la lucha contra el fraude proponiendo un plan conjunto

estamos en lo concreto haciendo planteamientos concretos y solicitando respuestas concretas para poder aprobar una reforma tributaria y un plan de lucha contra el fraude fiscal en un tiempo concreto señor maneiro estamos hablando de lo concreto

podemos realizar un claro ejercicio de responsabilidad pública mi objetivo ha sido claro con la doble convocatoria a las instituciones públicas y a los partidos quería que todos los responsables institucionales y políticos de este país
pudiéramos compartir diagnóstico y bases para una actuación conjunta eskerrik asko lehendakari jauna

conseguir su complicidad y su liderazgo en un asunto que a juicio de los socialistas vascos ha pasado de ser un problema a convertirse en un escándalo

de la explotación y de la vida útil más la prórroga que se concedió de dos años a la central tampoco es consecuencia de una opción energética

el suministro energético para la población tampoco esta decisión hoy en revisión es consecuencia de una decisión sobre la situación

la decisión de nuclenor de solicitar el mantenimiento de su explotación se reduce a las expectativas de lucro que hace meses creyeron no tener y que hoy

con nosotros que esto planteado así que es como se ha planteado es un auténtico escándalo

de forma irresponsable a alentar esta pretensión de nuclenor obviamente no estamos ante un concurso de coincidencias

sino que aquí hay una expectativa de negocio propiciada por el gobierno rajoy mediante una necesaria promesa de revisar y cambiar la política fiscal

y hoy le lleva a decir que sí y el escándalo se multiplica cuando se sabe a los técnicos que estaban trabajando en el cierre desmantelamiento y tratamiento de los residuos radiactivos por sorpresa en estos últimos días de manera

sin tiempo y sin medios para hacerlo se despide un pronunciamiento sobre su continuidad el espectáculo del consejo de seguridad nuclear

sobre este más que temerario cambio político del gobierno de españa y de nuclenor es un reflejo de improvisación inseguridad e insensatez

con ocultación a la sociedad vasca a sus instituciones y a sus intereses

de espaldas a las instituciones alavesas y a toda la ciudadanía

ni el diputado general de álava están al tanto de esto que rajoy no ha contado con ellos aunque también debo advertir a quien quiera escuchar

porque no defiende lo que sí defiende en esta materia la inmensa mayoría de la ciudadanía alavesa y vasca y de manera entrevista solo se atreve a decir que si al gobierno de españa se le ocurriera mantener abierta la central

explicaciones el diputado general de álava parece que no se ha enterado todavía que ni la ciudadanía alavesa ni la ciudadanía vasca no requerimos de explicaciones

del cierre de la central nuclear de santa maría de garoña

unitario a esta barbaridad a este riesgo de quedar atrapados en una central nuclear caducada que tiene todos los procedimientos y requisitos para ser cerrada y que solo el gobierno del partido popular de españa quiere evitar

energéticas de álava y de euskadi no puede quedar a merced de los beneficios económicos de nuclenor esta

del gobierno rajoy y de nuclenor necesita de una contundente respuesta de rechazo y los socialistas queremos

arrazoi batzuk y formulo lo mismo que acabo de decir en euskera en castellano claramente este gobierno quiere reiterar que mantenemos la misma postura que hemos mantenido favorable

por su obsolescencia y por seguridad en todo caso sí me gustaría repasar un poco la historia de esta central para ver donde hoy nos encontramos

y en julio de dos mil nueve expiraba su permiso de explotación y por eso la compañía propietaria nuclenor que está constituida además a partes iguales por endesa y por iberdrola como todos ustedes saben

la extensión de su vida útil durante diez años más es decir hasta dos mil diecinueve el gobierno español previo informe del consejo de seguridad nuclear

y todavía no ha adoptado ninguna decisión aprobó una prórroga de la explotación de cuatro años que finaliza

ahora el gobierno del partido popular quiere revocar esta orden

como pedían inicialmente las empresas propietarias y esto supondría que garoña alcance una vida útil de nada más y nada menos de cuarenta y ocho años

este gobierno se manifiesta contrario a la continuidad de esta central evidentemente favorable a su cierre en julio de dos mil trece como estaba previsto en primer lugar porque esta central nuclear de santa maría de garoña se puso en marcha como hemos dicho en mil novecientos setenta corresponde a las de primera generación de centrales nucleares instaladas en todo el estado junto con centrales como las de

que inició su actividad en el año sesenta y ocho o la de vandellós primero

en el año setenta y dos estas últimas han sido cerradas han terminado su actividad y han sido ya

fueron diseñadas y puestas en marcha con criterios de los años cincuenta y sesenta

y nuevos elementos de seguridad seguimos considerando que la central es obsoleta y por tanto procedemos o debemos proceder a su cierre porque a pesar repito de haberse realizado una serie de modificaciones conceptualmente

en segundo lugar además esta central con sus cuarenta y tres años de explotación ha sobrepasado sin duda el umbral de su vida útil su vida útil su funcionamiento

y en este momento consideramos que la solicitud de prórroga a partir de este año dos mil trece

esperando la resolución del consejo de seguridad nuclear no se debe producir en tercer lugar creemos que existiendo en la actualidad un parque de generación eléctrica seguro competitivo donde el mix energético está más o menos equilibrado desde luego el funcionamiento no aporta nada especial ni a la calidad del suministro

a todos y cada uno de los ciudadanos ni siquiera a las empresas que son las más afectadas en su competitividad por los precios de la energía por todo ello seguimos reiterándonos en el rechazo al funcionamiento de esta instalación en estas condiciones

en todos los foros a los que tiene acceso y en los que está presente en el marco de sus competencias evidentemente en la postura contraria a la continuidad de esta central y su postura favorable al cierre tiene sentido que mantengamos en funcionamiento esta central que ya ha cumplido más de cuarenta años con una tecnología ya obsoleta una central de primera generación que no aporta nada especial al mix energético nosotros creemos que no

se ha manifestado en reiteradas ocasiones siempre contrario a esta prórroga hemos defendido siempre el cierre de esta central y así lo hace este gobierno en la primera ocasión que tiene de establecer su postura en este parlamento por tanto no voy a argumentar más en este aspecto

en el que no hemos comentado pero me gustaría también entrar y es enla consideración que se merecen los municipios

defenderemos por tanto tanto el cierre de la central nuclear como que se pongan en marcha por parte del estado medidas

de toda esa zona para la que los efectos negativos del cierre de la central

más desempleo y peor situación económica que la que ya viven en este momento por tanto además de cierre de la central exigiremos medidas compensatorias para los municipios del entorno

elkarlanerako jarrera bat el gobierno por lo tanto señor matute considero importante destacar también lo que ha hecho hasta ahora ha actuado y va a seguir haciéndolo de acuerdo con el resto de instituciones públicas y lo subrayo como hasta ahora en lo que corresponde al gobierno concretamente primero ayuda económica

una ayuda de primera necesidad destinada a normalizar la vida de las personas que se vieron afectadas

el objeto de la ayuda era facilitar a estas personas ropa productos de primera necesidad y enseres del hogar segundo alojamiento

o casas de parientes y amigos el viernes trece de abril se pusieron a disposición del ayuntamiento

ocho viviendas del parque de alquiler del gobierno vasco para acoger a estas familias y tercero rehabilitación el gobierno se ha comprometido con el ayuntamiento de bermeo a contratar y pagar los proyectos de ejecución

conocedores de los condicionantes que existen perdón matute tantas veces las intervenciones del señor maneiro señor matute le pido perdón insisto somos conocedores y conscientes de los condicionantes

si con ello y con el análisis de la situación desde las instituciones competentes se estima pertinente la solicitud de ayuda

pero insisto hemos de ser conocedores y conscientes como lo somos en el caso del gobierno vasco de los condicionantes que existen en la consideración

la equivocación habrá sido por la reiteración o por la insistencia de los temas de la de la persona aludida y no por la coincidencia ideológica eso sí me preocuparía y en ese caso quizás no podría aceptar tan de buen grado las disculpas únicamente aclararle

nosotros no hemos puesto en tela de juicio el papel del gobierno vasco ha llevado a cabo

en ningún momento nosotros hemos puesto en cuestión el trabajo del departamento de viviendas somos conscientes de la labor que quiere realizar

sí que creemos que esa rehabilitación es parcial o limitada si no atiende al conjunto de la rehabilitación del casco antiguo porque ahora mismo y aunque es cierto que la afectación se produjo en un número determinado de viviendas las consecuencias las está pagando no seré

que el conjunto de esa zona el conjunto de la calle por cuanto la estructura para mantener todavía habitable ese lugar para lo que no fue afectado por la vivienda está condicionando a los comercios y a los vecinos y casi

la rehabilitación de esa zona es importante porque yo creo que la rehabilitación integral del casco

lo es también y probablemente ahí haya que hacer un esfuerzo mayor pero en cualquier caso la pregunta tenía que ver con eso último que me ha contestado que es la declaración de zona catastrófica somos muy conscientes de los condicionantes que tiene pero también somos muy conscientes de que la declaración de zona catastrófica permite

el gobierno vasco tampoco como le gustaría o como desearía y únicamente para eso o no únicamente para eso pero fundamentalmente para eso es necesario

que determine que tal petición se ajusta a lo razonable y que por tanto puede procederse a la misma esa es

nos consta a diferentes miembros de este gobierno y que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de poder seguir

los niveles de ayuda que hasta la actualidad se han mantenido porque es cierto que la respuesta fue inmediata y rápida por parte de diferentes instituciones pero también es cierto que en esta como en otras muchas tragedias suele ocurrir que a la respuesta inmediata solidaria y casi en avalancha le acompaña un período de inasistencia o de desasistencia

va haciendo que se empeoren esas primeras condiciones y es lo que seguramente ni ustedes ni nosotros y nosotras

por eso planteamos esta cuestión yo no voy a utilizar más tiempo en referir lo que probablemente todos y usted

de familias afectadas que son treinta y siete o el número de edificios o comercios afectados lo que sí que vamos a plantear es la idoneidad siendo conscientes de que

con la magnitud o con la cantidad de personas afectadas pero entendiendo que también en el estado español existen precedentes que determinan que sí pudiera agarrarse a la afectación de declaración de zona catastrófica y por tanto beneficiarse de las potenciales ayudas esa declaración pudieran derivarse es eso lo que le pedimos al gobierno vasco y esa es la motivación de esta pregunta que se den los pasos necesarios que la dirección de emergencias emita la valoración que tenga que emitir

para que todas las peticiones que ya han realizado los vecinos que ya han realizado los comercios y que ya ha realizado el propio ayuntamiento

a qué camino pueden agarrarse si al de la declaración de zona catastrófica o a cualquier otro que se pueda habilitar besterik ez mila esker

con ellas dentro del ámbito de nuestras competencias lo hemos hecho todas las instituciones trabajando conjuntamente y el gobierno vasco en coordinación con el ayuntamiento y con la diputación foral de bizkaia en contacto permanente con el ayuntamiento

e insisto somos conocedores y conscientes de lo que son los condicionantes que existen en la consideración de zona

es nuestro compromiso para seguir ayudando en todo lo posible eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako

los socialistas no tienen necesidad de demasiada explicación por nuestra parte se trata de pedirle un pronunciamiento expreso si usted quiere hacerlo sobre

que tiene un enorme valor democrático en una sociedad como la vasca que tanto ha sufrido con el terrorismo de eta que es un valor también extensible a la ciudadanía en general pero muy especialmente para quienes hemos sufrido directamente las amenazas la persecución y los atentados

sobre política penitenciaria el pasado diez de mayo la otra sobre la defensa del estado de derecho y la sociedad democrática el pasado dieciséis de mayo en esta cámara quedó claro

terroristas y quiénes los consideran presos de motivación política lo que no quedó claro es lo que piensa y cómo define a los terroristas de eta

obviamente esta iniciativa no pretende resolver la posición de dicho grupo

representa institucionalmente y políticamente en este país

no tiene ninguna duda sobre su compromiso y trayectoria en la lucha contra el terrorismo como tampoco mi grupo no tiene ninguna duda sobre la necesidad

en la desaparición total de eta en la defensa de la memoria y dignidad de todas las víctimas y en el asentamiento de un relato cierto justo de los demócratas

lehendakari usted y yo sabemos y toda la cámara sabe que de unos pocos meses

existe un intento cada vez más reiterado por parte de bildu y su entorno de dulcificar la acción del terror y de vestir a los presos de eta con un ropaje no sé si épico si utópico o de semivíctima o de todo un poco para impostar y para recrear

a sus fechorías y sus mentiras y a través de las cuales poder explicar que también

a su violencia confluían distintas violencias que en definitiva terminaba justificando las suyas esta relectura de la historia tiene más gravedad que la aparente

y en estas expresiones políticas también se encuadran fuerzas políticas como aralar y eusko alkartasuna que a nuestro modo de ver están dando marcha atrás están desandando sus pasos y compromisos y cada día tiene un relato más cercano

parte de bildu lehendakari usted sabe que de lo que hablamos es de principios y valores de ética de principios valores y ética que no pueden estar a subasta o a conveniencia particular de cada cual porque si tal cosa sucediera la ciudadanía en general y las víctimas en particular

totalmente necesarios para la convivencia y la justicia lehendakari su pronunciamiento hoy aquí para nosotros tiene un sentido institucional que supera el ámbito político de cada partido que el lehendakari de todos los vascos y vascas dé tranquilidad y seguridad a la inmensa mayoría de la ciudadanía y muy especialmente a quienes han sufrido las consecuencias directas del terror

de circunstancias políticas o de terroristas puros y duros es una oportunidad y una necesidad que precisa

y que así se la pedimos eskerrik asko prieto jauna

le voy a ofrecer una respuesta y si me lo toma a bien le voy a realizar una propuesta la respuesta por mi parte y sin recurrir a declaraciones como la de la organización de naciones unidas u otras consideraciones que ya se hicieron la semana pasada en este foro en esta cámara la respuesta por mi parte es clara es preso político

quien está encarcelado por sus ideas cuando una persona está condenada por la comisión de hechos violentos que constituyen violaciones de derechos humanos y no por una defensa política de sus ideales no puede ser calificado como preso político a continuación si me permite

tenemos y sin ánimo de usurpar sino al revés de que las decisiones que se adopten en el pleno del parlamento vasco sean efectivas

que es la ponencia de paz y convivencia que hemos creado en este parlamento

por el debate de la semana pasada y por la pregunta que hoy me ha formulado probablemente

utilizar el término preso político ni usted me lo habría escuchado a mí tampoco seguro

que contribuyamos a promocionar y dar publicidad a la utilización de un término que pretendemos evitar por la consideración expuesta en mi respuesta beraz

sí para agradecerle la contestación y para decirle que seguramente ha reconfortado a muchas personas

en cuanto a que es la misma del grupo nacionalistas vascos euzko abertzaleak del partido nacionalista vasco por eso señor prieto insistiendo en lo que he dicho en mi planteamiento anterior en cuanto a abordar la cuestión de fondo de la convivencia y uno de los temas capitales que usted ha referido también en su primera intervención es la revisión crítica y severa del pasado

estos temas como arma arrojadiza de unos contra otros aun cuando usted considerara que era necesaria la explicación por parte del lehendakari agradezco

en todo caso hago mía la propuesta del grupo nacionalistas vascos euzko abertzaleak para remitir esta cuestión en su integridad a la ponencia de paz y convivencia creo que este es el lugar

con la profundidad que merece de forma que una vez alcanzadas unas conclusiones puedan ser presentadas y debatidas en este pleno yo creo que son evidentes

egun on lehendakari sailburuak guztioi los socialistas señora consejera estamos verdaderamente preocupados por el desempleo por la situación económica

y estoy seguro que usted también lo está sabemos que es imprescindible ser competitivos para poder mantener el empleo y la actividad de las empresas

creo que deberíamos compartir la necesidad de impulsar el desarrollo

con productos de alto valor añadido nuestra decisión la de los socialistas se vio la pasada legislatura el gobierno socialista puso en marcha programas y reforzó otros

se aprobó el plan de competitividad empresarial dos mil diez dos mil trece y el plan de ciencia tecnología e innovación dos mil quince que incluye el objetivo de alcanzar una inversión total pública y privada del tres por ciento del pib en bi mila hamabost

ejemplos principales en dos mil diez se alcanzó la media de la unión europea de los quince por primera vez en euskadi

además de investigación innovación e internacionalización destinándose seis de cada diez euros del departamento

a través del programa marco que supusieron el dieciséis coma dieciséis por ciento

en toda españa aunque nuestro pib es solo el seis por ciento del español ahora que ustedes continúen esta senda porque hace falta necesitamos

pero las actuaciones no se ven en las declaraciones sino en los presupuestos donde se expresan las políticas con la financiación mire el gobierno socialista con un presupuesto en dos mil doce inferior al de dos mil nueve aumentó cuantitativamente el gasto

pero que indica su intención política los fondos para el departamento

un veinticinco coma nueve por ciento en comparación homogénea lo que era industria la legislatura pasada en el dos mil doce y en esta

se reducía de manera muy importante el apoyo a los agentes de la red vasca de ciencia tecnología e innovación

es el fondo y el problema del debate y sobre todo del país tanto el lehendakari como usted llevan

alrededor de cinco áreas entienden prioritarias de actuación entre las que están para lo que nos ocupa hoy

y el impulso a la innovación pero esas intenciones son contradichas por los presupuestos que ustedes habían previsto para el dos mil trece algunos ejemplos

disminuyen ochenta y ocho millónes de euros respecto a dos mil doce

de las empresas y de los centros tecnológicos todo ello englobado en tres grandes apartados

que se ocupa del desarrollo e innovación en las nuevas tecnologías en las tics que baja un sesenta coma tres por ciento

y estrategia de competitividad fíjese donde están poniendo énfasis en las declaraciones innovación y competitividad

ya quita cuarenta y cuatro millónes así que todo el dinero destinado a lo que usted dice que es importante

de forma drástica cómo lo van a hacer entonces a parte de las declaraciones las empresas están esperando y necesitan un gobierno que actúe no que haga declaraciones otro caso fundamental es el fondo de innovación

precisamente el fondo donde está la investigación básica los bercs y los cics y parte de la investigación estratégica de los etortek

un caso que me parece muy significativo de la contradicción del discurso y los hechos

es la reducción a la mitad de la dotación para el convenio de centro tecnológico aeronáutico un sector estratégico en euskadi con el agravante de que no se cumple el crédito de compromiso que era de trescientos mil euros queda en la mitad

prevean sus planificaciones en función de lo que la administración les dice que les va a dar al ejercicio siguiente a la mitad ciento cincuenta mil euros menos y también por ver la magnitud del desastre en su conjunto

incluyen como objetivo la ejecución del plan de ciencia tecnología e innovación

se trata de llegar al tres por ciento del pib en bi mila hamabost y cómo lo

si solo el fondo de innovación debería tener setenta millónes este año y le han asignado treinta y cinco millónes y disminuye el conjunto

pero como quiero hacer

voy a saltarme otros ejemplos y quiero decirle que el problema no es solo que recorten sino que han eliminado programas por ejemplo

un programa que apoya la investigación estratégica para mejorar la competitividad de las empresas destinado directamente a los agentes de la red vasca de ciencia tecnología e innovación y lo quita

de él y con qué lo va a sustituir porque

dónde está el impulso a la investigación al desarrollo y a la innovación que son imprescindibles si queremos tener futuro el caso es

nivel tecnológico necesitamos aumentar la competitividad

con lo que la mejora de la competitividad está viniendo únicamente por la bajada de los salarios

la posibilidad de despidos en los agentes de la red vasca de ciencia tecnología e innovación

una pública y otra bajo contrato con empresas y por las dos vías le reducen ustedes los fondos

la financiación directa del gobierno vasco para estos agentes disminuye además de los recortes de madrid y de una mayor competencia en la lucha por los fondos europeos

si la administración oferta pero disminuye esa oferta y entonces las empresas no entran estamos hablando de un colectivo descontada la universidad

lo que hará que las empresas estén más débiles para salir de la crisis y provocarán paro incluso directamente por eso le pregunto si va a mantener usted

de la red vasca de ciencia tecnología e innovación en los niveles que tenía en dos mil doce lo que implica también mantener los programas que ha decidido eliminar no le pido que aumente sino que mantenga el esfuerzo

tiene un presupuesto prorrogado en el que están todas las partidas con su dotación del presupuesto del dos mil doce todo eso está a su disposición porque hay que compartir un proyecto para euskadi ha dicho el lehendakari hace unos momentos pero qué proyecto

ese proyecto no lo podemos compartir mire usted al presupuesto que tiene aprobado que es el socialista

la red vasca de ciencia tecnología e innovación tiene muchos agentes dentro de ella pero la parte que corresponde al departamento de desarrollo económico y competitividad se refiere a los centros tecnológicos como usted sin duda conoce los tics

son herramientas del departamento dedicadas al desarrollo industrial como usted bien ha dicho y al aumento de la competitividad del país aclararlo creo que suele venir bien a veces

egindako esfortzua guztion artean egindakoa se trata por tanto de un propósito en el que hemos venido trabajando desde hace muchas décadas desde el inicio del gobierno vasco y también en estos meses de legislatura en todo caso

que es el objetivo del departamento requiere a nuestro juicio un análisis cuyo diagnóstico nos obliga a reconducir algunos aspectos

y no nos debemos olvidar actualizar por tanto el papel de los distintos agentes de la red y por tanto

en todo ese ámbito encaminada al desarrollo de los ámbitos prioritarios para euskadi por supuesto evidentemente resulta necesario abordar la eficiencia de los recursos públicos que destinamos a este ámbito eficiencia que no depende tanto del cuánto sino del cómo se destine y se gestione euskadi se ha caracterizado durante los últimos años por los esfuerzos que ha realizado en la inversión

sin embargo esos esfuerzos como usted bien conoce no se han visto recompensados con resultados de retornos

por tanto a pesar de que hemos logrado que nuestro sector económico sobre todo el industrial ofrezca productos

valor añadido nos toca optimizar las herramientas que tenemos

mucho más importantes que los que existen en la actualidad en la red vasca de ciencia tecnología e innovación nuestra mirada como lo he dicho en más de una ocasión

pero sí queremos abordar cuanto antes y así lo estamos haciendo la eficacia del sistema

esa estrategia en la que todos estamos de acuerdo y evidentemente continuamos con el compromiso en el que creo que también estamos de acuerdo de la inversión encaminada

y me gustaría reiterar que no es solo pública sino que es pública y privada y que en la medida en la que nuestros centros tecnológicos solo

en cualquier memoria suya aparece solo el treinta por ciento de la financiación es pública tienen un esfuerzo muy importante que hacer en la financiación privada

nacen inicialmente solamente con financiación pública

objetivo que aún no han cumplido la mayoría de ellos creo que ahí tenemos mucho

tenemos que enfocarlos a aquellos ámbitos competitivos donde los esfuerzos realizados obtengan mayor rendimiento haciendo una gestión responsable de los recursos que destinamos a la investigación real y a lo que se obtiene como retorno y desde luego haciendo una gestión

porque nos hacemos un poco de trampas no es el presupuesto aprobado de dos mil doce el que se prorroga es el presupuesto ejecutado de dos mil doce el que se prorroga es decir

y si no queremos hacernos trampas todos sabemos que durante el ejercicio pasado y antes de su ecuador los departamentos también en el que en aquel momento era industria y donde se encontraba esta

en la que ahora está en el departamento de desarrollo económico y competitividad procedieron a las retenciones de créditos sobre sus propios presupuestos

efectivamente este gasto ejecutado en cierre del ejercicio fue notablemente inferior

al del presupuesto que figura como registrado en esta cámara en este sentido

procederá a gastar en este ejercicio como límite el importe de gasto que tenía asignado en el presupuesto en el anteproyecto de presupuestos que presentamos en el dos mil trece porque no podemos gastar lo que no tenemos no nos podemos hacer trampas eso es hacernos trampas al solitario y no puede ser en cualquier caso

más que posible relajación del déficit y mayor disponibilidad de recursos los acuerdos que se están trabajando en la mesa interinstitucional liderada por el lehendakari de cara al destino de esos recursos estamos trabajando que existan mayores recursos para la tecnología entre otros aspectos

ese cta del que usted estaba hablando y también el lehendakari lo ha dicho en más de una ocasión existe prevista una partida de veinte millónes de euros dedicada exclusivamente

en cualquier caso sí me gustaría ahondar en un aspecto y es que

en el anteproyecto de presupuestos de este ejercicio figuraba un montante global en su conjunto

superior a los ciento cincuenta y siete millónes de euros a los que hay que añadir dos partidas importantes veinte millónes procedentes del fondo de innovación

y otros veinte millónes de euros que hemos asignado aunque no estén incorporados al presupuesto del departamento sino que están asignados

como en redes inteligentes como en otros aspectos de eficiencia energética por tanto si sumamos todos estos montantes y

tenga usted por seguro señor reyes que no solo vamos a igualar el presupuesto ejecutado en dos mil doce sino que además lo vamos a superar y por cierto

sí sale el que no hemos previsto y prevemos después trabajarlo

el que figura en este momento en el anteproyecto de presupuestos como que no sale gracias eskerrik asko

lo que sale en consejo de gobierno dieciséis millónes sí pero como ponía en la memoria y como usted me reconoció en la comparecencia parlamentaria

desaparece lo ha sacado con los créditos de compromiso del año pasado no hay convocatoria nueva con un importe muy inferior al que estaba en los créditos de compromiso del año pasado y eso

magnífico mire dice que el objetivo

a euskadi en el ámbito de la investigación y habla de

pero hay programas en marcha que disminuyen y programas en marcha que desaparecen y no hay programas nuevos dedicados

a los centros tecnológicos no hay le voy a comparar porque la realidad es muy tozuda solo algunos ejemplos

las memorias de los dos presupuestos del dos mil doce y del dos mil trece gaitek por ejemplo el número de empresas apoyadas en proyectos de competitividad

cuatrocientos veinte doscientos treinta proyectos menos el número de proyectos de competitividad

en dos mil doce seiscientos sesenta y en dos mil trece laurehun doscientos sesenta menos y podemos hablar de la ejecución

cumplidos número de proyectos de competitividad puestos en marcha en dos mil doce cuatrocientos en dos mil trece doscientos noventa puestos en marcha con

un desfase de ciento diez ikertu para incorporar personal

setenta personas dos mil doce cero porque desaparece en dos mil trece

nueve menos como yo le digo solo con los créditos de compromiso y menos de lo que había y por ámbitos de investigación doce ámbitos en el dos mil doce y nueve en bi mila hamairu

en dos mil doce se presentaron más proyectos de los estimados en la memoria y en dos mil trece aumentarán seguro por la crisis

cuando les deniegue después de tanto discurso esos proyectos y estamos a finales de mayo y eso no es analizar y eso no es

es que no van a tener ese dinero y el efecto va a ser bajar la competitividad bajar aún más nuestra competencia tecnológica y aumento del paro en el caso de proyectos de competitividad

más que el año pasado y tiene previstas cuatrocientos tendrá que decir que no a mil a algunas empresas grandes les va a decir que son malos porque los tiene que seleccionar se lo tendrá que decir

habla de análisis estamos a finales de mayo para mejorar para gestionar mejor

no iban a llegar e iban a ponerse a reglar el país que estaba estropeado por lo visto es que se va el año y las empresas no pueden esperar

pues hágalo haga un plan pero mientras tanto meta dinero para que no se muera

participación pública y privada ya se lo he dicho yo y está en el pcti pero la responsable del gobierno es incentivar la participación privada

felicitarla porque ha conseguido avanzar y

cuando fueron las elecciones que no se ejecutará más

porque querían desde el principio en algunos proyectos y algunas cuestiones actuar pero mire

lo que tienen si ustedes antes del dos mil nueve se endeudaban con una alegría impresionante

pero hay que incentivar la economía y de hecho están pensando en endeudarse si la relajación del déficit se produce en qué quedamos

va a meter usted por lo menos los ochenta millónes que falta lo vista como lo vista para

eskerrik asko presidente andrea vamos a aclarar un par de conceptos

etortek porque me está liando con el etortek vamos a ver los créditos de compromiso de etortek para dos mil trece son once millónes exactamente

y la convocatoria que hemos sacado este año dos mil trece dos mil catorce no de tres años sino de dos años solamente con dieciséis millónes más por tanto

vale de todas formas hablaba usted de números de proyectos

una empresa sabe que no es lo mismo cantidad y calidad es decir

claro he repartido a mil proyectos he financiado mil proyectos sin embargo quizá es mejor priorizar

a muchos de ellos priorizar y decir que si a diez y repartir cien euros a esos diez porque realmente lo que genera competitividad y lo que genera nuevos productos

no me mezcle cantidad con calidad de producción y con calidad de proyecto que se ha presentado no me gustaría

hay que hacer que esa financiación sea suficiente como para que el proyecto se lleve adelante y tenga resultados es cierto que hay dos proyectos dos programas importantes que no han salido y que pretendemos poner en marcha a lo largo del año con esa relajación del déficit y son como usted bien dice el saiotek y el ikertu

en este caso a los que dependen del departamento sino a todos los agentes de la red vasca de ciencia tecnología e innovación

es un programa importante que pretendemos llevar a cabo así como

de capital humano son los dos programas que no han salido y sin embargo sí es importante llevarlos a cabo usted me dice

la única retención que se solicitó es que no se estableciera un nuevo fondo de innovación dos mil trece en adelante que ese

sin salir que no establecieran ese fondo de innovación el resto de las retenciones de crédito

mucho antes de producirse las elecciones por tanto sí es cierto que el fondo de innovación se ha reducido y hemos puesto en marcha uno distinto pero no es cierto que esa retención de crédito se haya producido por ninguna exigencia la retención se había producido en el gobierno

luego los ochenta y ocho millónes que faltan señor reyes son respecto al presupuesto aprobado me está hablando de memorias memoria memoria no señor reyes en la prórroga es ejecutado sí la prórroga es respecto a lo ejecutado y es bien distinto

lo ejecutado en el año dos mil doce los veinte millónes del fondo de innovación más los veinte millónes del eve y se le suma los veinte millónes que esperemos además lleguen

actuaciones dirigidas dentro de la red vasca de ciencia tecnología e innovación con el resto de instituciones

usted y yo coincidiremos en que sea ejecutado

realmente la red vasca de ciencia tecnología e innovación está haciendo lo que tiene que hacer nada más y ellos saben además que lo tienen que hacer

se encuentra entre las prioridades de este gobierno no lo ponga usted en duda en todo caso

al gobierno a este gobierno debería ser compartido a nuestro juicio por el resto de instituciones no solo ahora también previamente en las que ciertas instituciones gobernadas por el partido socialista en su momento

responsabilice a este gobierno de actuaciones que tenían que haber llevado a cabo en determinado momento y ahora aprovechando que hay menos recursos
públicos los privados no hagan lo que tienen que hacer eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea denbora amaitu zaizu